gracias señora presidenta buenos días a todas y todos euskarari dagokion guztia uste dut oso emozionala dela denontzat

buenos días señoras señores parlamentarios yo realmente utilizaría

pero como el resto como hace el resto de grupos parlamentarios pero debido al cordón sanitario me veo obligada a utilizar el turno en contra para de esta manera contar con el tiempo necesario

de eh bildu tener derecho siempre se considera una ventaja un añadido que nos da la posibilidad de estar insertos dentro de un estado nación fuerte que garantiza esos derechos

son solo papel mojado la proposición de ley que ha traído a esta cámara eh bildu busca abundar en el derecho de la población vasca para estudiar y comprender el euskera

el batua en vox al contrario de lo que suele decir la izquierda divagante y los secesionistas no tenemos ningún problema con la lengua más bien al contrario la valoramos como uno de los grandes hitos de la cultura española

en la necesidad de su estudio a todos los niveles sin embargo no podemos caer en la ingenuidad ante la propuesta de bildu pues basta leer una vez su iniciativa para saber que en realidad lo que buscan no es garantizar el derecho sino todo lo contrario obligar a la población

si no a la necesidad de construir en torno a una lengua lo que benedict anderson llamó comunidades imaginarias

no puede dejar de lado la realidad de que durante muchos años ha dado alas a los dos nacionalismos tanto el catalán como el vasco por su lado el psoe ha sido simple y llanamente el gran arquitecto de este desaguisado podríamos decir que para ellos no es ningún problema da fe de ello la noticia de haber pactado con bildu los presupuestos un partido cuyo único objetivo es tumbar el régimen volviendo al tema que estamos tratando la iniciativa de bildu no debemos de pasar por alto que impone la obligatoriedad de terminar la eso con un nivel be dos

señoras y señores de podemos y psoe no se dan cuenta de que esta obligación solamente

sobre todo lastra a las clases más humildes no es un dato que nos inventemos desde vox

dicen que la peor es la vasca y digo la peor en cuanto a diferencia entre nativos la razón obviamente el euskera la educación obligatoria no debe ser una prueba para ver quién es más y mejor euskaldun es una fase en la que nuestros jóvenes deben dar cuenta de un determinado nivel de conocimientos

matemáticas geografía ciencias algo que para ustedes por lo visto no tiene ninguna relevancia y entre las cuestiones que deben garantizar las administraciones quiero destacar una

el castellano es la lengua española oficial del estado todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla por lo tanto lejos de obligar a nuestros jóvenes a acreditar un nivel be dos para obtener la eso

trabajaremos para hacer obligatorio a todos los alumnos que cursen la educación obligatoria en euskera

por último no quiero más que recordar la realidad de las empresas privadas

por más que se empeñen en las empresas privadas no consiguen que el nivel de euskera que ustedes quieren entre y allí donde lo consiguen solamente logran hundir la competitividad de estas basta recordar las denuncias de varios sectores ante la imposibilidad de encontrar mano de obra cualificada por las exigencias en euskera

porque han hecho de euskadi y de su mundo laboral un entorno endogámico poco atractivo para la atracción de talentos

respeten nuestra diversidad respeten la pluralidad de las tres provincias con sus semejanzas y sus diferencias sobre todo respeten el idioma mayoritario de los vascos

y sobre la que construir un futuro brillante euskera y español no deben estar en conflicto aunque sabemos que de eso viven muchos de ustedes derecho a saber euskera

gracias presidenta lehendakari consejero consejeras

ya hicimos en la tramitación de esta misma iniciativa en la legislatura anterior mi grupo

de ley entendemos que no es necesaria una ley como la propuesta y más después de leer el criterio desfavorable del gobierno en relación con los instrumentos y las medidas que la administración pone en manos de unos ciudadanos es decir con el criterio con el punto b del criterio del gobierno pues yo creo que se tendría que haber retirado la iniciativa el punto b

consolidadas eso dice el gobierno en las políticas y programas del departamento de cultura y política lingüística así como de otros departamentos

para su debida ejecución esas medidas ya implantadas y otras previstas programadas para la legislatura doce

por eso mismo el hacer un debate en relación con una proporción de ley y hacer una ley pues se nota y se ve absolutamente innecesario

buscando la iniciativa una permanente politización del euskera forzar debates que no existen en la sociedad y utilizar la lengua como un argumento político al margen de necesidades y de realidad busca también forzar realidades educativas

deben de existir en esa medida o sea que yo creo que no es necesaria en ningún momento por eso

hemos votado en contra está claro que es una regulación innecesaria

a la cantidad de instrumentos educativos culturales financieros subvencionales de los que dispone esta comunidad en relación con el aprendizaje y uso del euskera son innumerables las oportunidades y las posibilidades de aprender esta lengua ayudas públicas redes amplias de academias euskaltegis y escuelas de idiomas que ofrecen este servicio oferta educativa y universitaria cada día más perfeccionada y completa en relación con lo propuesto

en las personas adultas además no puede depender de un gratis total que dejaría de favorecer otras prioridades públicas de mayor importancia y sobre todo en un momento crítico en un momento tan complicado como este que vivimos

de sus adiestramientos lingüísticos o culturales está en que esas personas lo decidan y de sobre es conocido que aquellas personas con dificultades económicas pueden acceder a ayudas y subvenciones para su euskaldunización

que la población además y habría que consultárselo prefiera otros gratis totales autobuses

mascarillas u otras formas de acceso a la cultura pero todo es inviable en relación con la iniciativa y sobre todo con el preámbulo

no es verdad que el estatuto de autonomía del país vasco

como se dice en el párrafo primero de la justificación para ser rigurosos el estatuto de autonomía del país vasco en su artículo seis dice que tanto el castellano como el euskera son lenguas oficiales en euskadi y que todos sus habitantes tienen el derecho a conocer y a usar ambas lenguas eso lo dice muy claro no es verdad

literalmente el artículo cinco punto uno del texto legal citado dice

que es muy distinto y en tercer lugar no es preciso ni completo lo afirmado en el párrafo tercero de la proposición con respecto a que el estatuto de autonomía del país vasco en su artículo seis punto dos señala que las instituciones comunes canalizan y regularán

el artículo seis punto dos del estatuto de autonomía del país vasco establece que las instituciones comunes de la comunidad autónoma teniendo en cuenta la diversidad sociolingüística del país garantizarán el uso de ambas lenguas regulando su carácter oficial y arbitrarán y regularán las medidas y medios necesarios para asegurar su conocimiento

obligación de garantizar es la posibilidad de uso no el conocimiento lo que se arbitrarán y regularán para asegurar el conocimiento son medidas y medios

iniciativa es absolutamente prescindible muchas gracias eskerrik asko barrio jauna euskal sozialistak andueza jauna zurea da hitza

bizi nahi badugu bueno y no por paradójico y para terminar bueno me parece paradójico aquí he escuchado más de una vez que bueno parece que los únicos que somos bilingües

los únicos que sabemos las dos lenguas y los que solo saben una lengua sean los que parece ser sean las víctimas en

egun on denoi egun on legebiltzarkideok la falta de personal

el agotamiento físico y emocional la sobrecarga sistemática de trabajo

descuido de la salud laboral y nula disposición ante las necesidades de conciliación son algunos de los motivos que han esgrimido que han llevado

para realizar tres huelgas generales por territorio histórico durante las últimas

las y los profesionales de la sanidad denuncian además la ausencia de diálogo y la carente política sobre negociación colectiva que en los últimos años

vasco creemos que ante la convocatoria de esa huelga general que se ha llevado a cabo en la sanidad pública vasca es el momento de que el gobierno vasco una década de dar la espalda a las reivindicaciones de los sindicatos de la sanidad pública porque lo que está en juego junto a sus condiciones laborales es la calidad de nuestra sanidad pública con lo sucedido desde el pasado mes de marzo

no podemos admitir que las reivindicaciones de quienes han mostrado tal grado de compromiso ante la ciudadanía respondan a intereses peregrinos

o simplemente lo hagan alentados por no sé qué malévolas intenciones políticas de los sindicatos menos aun cuando la protesta es general coinciden en ella todos los sindicatos grandes y pequeños los sindicatos de clase pero también los sindicatos profesionales ela lab comisiones obreras ugt esk satse sindicato de enfermeras

médico de euskadi todos si en un momento tan delicado como este esos mismos profesionales han decidido apostar por realizar huelgas es decir apostar por el último recurso que tienen siempre las y los trabajadores para defender sus derechos y más aún lo han hecho

de estas huelgas es mayor que en cualquier otra situación es porque llevan muchos años alzando la voz y encontrándose con un muro en el gobierno vasco ante sus demandas

en el pleno de control del pasado treinta de octubre interpelamos a la consejera de salud sobre la respuesta que creía conveniente dar a los planteamientos

porque pensamos que el gobierno vasco tiene que dar una respuesta ágil y potente a quienes se vienen jugando la vida desde marzo por la salud

en materia de sanidad un programa de gobierno que ya conocían los convocantes de la huelga cuando convocaron una respuesta por lo tanto decepcionante para quienes vienen denunciando que el modelo de sanidad del gobierno vasco es el que está deteriorando la sanidad pública en euskadi

el gobierno lleva años precarizando las condiciones de trabajo del personal de la sanidad pública vasca años de recortes abiertos y encubiertos años de pérdida de peso de los recursos que se destinan a sanidad los profesionales

trabajadoras y trabajadores que en los últimos meses han salido a la calle a decir abiertamente que hasta aquí han llegado no deberíamos confundirnos no es solo la pandemia la que tiene cansados extenuados y hartos al personal

sino la década larga de confrontación con un gobierno que impulsa en sanidad las políticas contrarias a las que reclaman quienes sostienen la sanidad pública con su trabajo cotidiano trabajadores y sindicatos

al que hay que sentar en mesas de negociación a base de constantes movilizaciones de un gobierno que miente descaradamente sobre su relación con los sindicatos asegurando que negocia cuando apenas informa un gobierno que cuando alcanza con los representantes de los trabajadores se permite también el lujo de incumplirlos sin duda la actual crisis sanitaria ha agravado

de los últimos años y el debilitamiento progresivo del sistema sanitario los que verdaderamente han lastrado la respuesta al coronavirus y los que han provocado que en estos momentos el personal diga que está realizando su labor en condiciones extremas iremos por partes

pública nosotros proponemos equipararnos a la media de la unión europea y destinar el veinticinco por ciento real del presupuesto de sanidad a la atención primaria

lo hemos dicho en alguna ocasión la comparación con otras realidades sin tener en cuenta la riqueza de cada territorio

la cuestión no es solo cuántos miles de euros se gastan en salud pública porque dependen de cuántos millónes de euros disponga un territorio sino cuánto supone esto del total de la riqueza del país

de la unión europea claramente por debajo

europea en su informe de análisis de la situación de los sistemas sanitarios de la unión europea es decir el informe que analiza cómo son cómo están los sistemas sanitarios en los países de la unión europea dice que el gasto medio es cercano al diez por ciento en el estado español un punto por debajo cercano al nueve por ciento pero dice también que en euskadi apenas superamos el cinco por ciento estamos muy lejos hay que decir también hay que hacer perdón un esfuerzo presupuestario apostando por la sanidad pública pero además es verdad no se puede hacer de cualquier manera dedicar el veinticinco por ciento del gasto real de sanidad a la atención primaria evitaría sobrecargas y sobrecostes en el ámbito hospitalario evita la evolución y complicación de patologías

es fundamental en términos sanitarios pero también

económicos dedicar los recursos públicos necesarios a la atención primaria para reducir las listas de espera y garantizar la calidad y accesibilidad en las consultas de medicina y enfermería

junto a la inversión aunque obviamente ligada a esta la plantilla

ha demostrado que no tiene la plantilla suficiente pero sobre todo ha demostrado que tiene una plantilla en condiciones de precariedad con un nivel de temporalidad inaudito e inaceptable que se ha ido manteniendo y consolidando como estructural porque la política del gobierno vasco así

el objetivo tiene que ser en nuestra opinión garantizar una plantilla estructural adecuada porque en estos momentos no la tiene tiene una plantilla estructural infradotada y una plantilla eventual desorbitada en relación

las consecuencias de esta falta de personal y del alto grado de temporalidad en nuestro sistema de sanidad pública inciden de manera directa tanto sobre la calidad de nuestra sanidad es decir sobre la salud de la ciudadanía como sobre la calidad del empleo de miles de mujeres y hombres en euskadi nos hablan

inasumibles por parte de las y los profesionales algunas cifras médicos y enfermería no pueden dedicar ni diez minutos a cada paciente

en algunos períodos cuarenta y cinco los auxiliares administrativos a una media de cien

la sobrecarga de trabajo del personal viene siendo denunciada desde hace años son previas a la aparición del virus el cual lógicamente agudiza más

también sabemos que muchas veces no se sustituye a los profesionales en bajas vacaciones etcétera que la espera para ser atendido venía siendo cada vez mayor una media de cuatro días hace año y medio cuando los sindicatos convocaban movilizaciones en la atención primaria por esta misma cuestión

también de esta falta de personal y la alta interinidad los profesionales se ven obligados a realizar funciones que no les corresponden y que repercute también en la atención además de ser una vulneración de sus derechos laborales cuando la presión se hace grande por parte de los profesionales

el gobierno vasco anuncia algunas plazas que en realidad no son tal sino que son muchas veces contrataciones no negocia con los sindicatos cuántas ni cómo porque solo le importa el anuncio de las mismas las cuales luego vemos que apenas sirven para cubrir

existentes en estos momentos con el alto nivel de bajas producido por el covid todas las últimas contrataciones apenas alcanzan para eso para cubrir bajas por lo tanto no son solución a un problema de falta de plantilla y sobre todo de falta de plantilla estructural y exceso de temporalidad

creo que ya ha quedado demostrado y que sabe todo el mundo que las plazas anunciadas por el gobierno vasco para el periodo dos mil veinte dos mil veinticuatro con esas plazas no se soluciona que apenas van a servir para cubrir jubilaciones nosotros nos preguntamos cuáles cree el gobierno vasco que son las necesidades en cuanto a plantilla qué plantilla estructural cree el gobierno vasco que debe tener

en opinión del gobierno vasco no lo sabemos se actúa sobre la marcha y sirve además para hacer anuncios propagandísticos de vez en cuando en el teleberri no hay más no sabemos cuál

todos los sindicatos que están pasando estos días por la comisión de salud también echan en falta que exista esa planificación en tercer lugar traemos en nuestra iniciativa la cuestión de las privatizaciones y así las vamos a llamar por mucho que le moleste al gobierno vasco

no son privatizaciones estamos hablando de servicios sanitarios y también de servicios no sanitarios

comedores lavandería o los servicios de limpieza que han demostrado durante esta pandemia que no pueden ser entendidos como algo ajeno como algo complementario al sistema público de salud en nuestra opinión no puede haber negocio privado con los servicios públicos y menos aún con un servicio como la sanidad pública un derecho básico y fundamental para la gente de este país

y reivindicamos la puesta en marcha de los mecanismos necesarios para garantizar una sanidad pública integral hablamos también de servicios netamente sanitarios o es que acaso no gastamos millónes de dinero público en atención a pacientes en clínicas privadas actuaciones sanitarias que perfectamente podría y debería hacer osakidetza si se le dotarse de los recursos adecuados no deberíamos en nuestra opinión dedicar

para atención en clínicas privadas sino destinar los recursos necesarios para garantizar la atención completa en los centros públicos tampoco estamos de acuerdo con el modelo de privatización de una parte del transporte sanitario de las ambulancias

o no en nuestra opinión son parte de la sanidad pública y no hay razón alguna para un modelo de adjudicación de servicios a empresas privadas muchas de las cuales por cierto han demostrado en este sector no pocas malas prácticas especialmente en el trato a las y los trabajadores

ejemplo de un gran modelo treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve no hace tanto diario el correo poco sospechoso de ser amigo mío titular una de las empresas

abandona el servicio esta media noche el departamento de salud ha contactado con otras compañías para que cubran esta salida y no dejar las emergencias desatendidas

suponemos que este es un excelente ejemplo de la colaboración público privada el sector privado de las ambulancias vive a costa de dinero público

y las operaciones de absorciones fusiones compras etcétera apuntan a la cada vez mayor presencia de grandes grupos y la entrada de operadores internacionales son empresas

eso es así y no se puede permitir en nuestra opinión que el negocio prime cuando estamos hablando de un servicio público de primer orden

que busque sus clientes en el ámbito privado nada ni nadie se lo va a impedir pero no a costa de lo público y para finalizar instamos al gobierno vasco a sentarse a negociar de manera urgente con los sindicatos porque a este gobierno le cuesta sentarse a negociar y hay que arrancarle

las mejoras en las condiciones de trabajo y las mesas de negociación han tenido que convocar esta vez otras tres jornadas generales para tener fecha para una primera reunión negociadora pero finalmente no será esta semana sino la que viene casi como a las patronales más duras del ámbito privado cuando un gobierno debería tener

a estar en relación estrecha con los sindicatos lo mínimo que se le debe exigir al gobierno tras tres duras jornadas de huelga general en osakidetza

es que se tome en serio el papel de los sindicatos de la sanidad pública y que se sienten en serio para buscar acuerdos que den respuesta a sus demandas no puede seguir siendo la tónica

para que cada vez que estos pasan por la comisión de salud como ayer mismo escucharles a todos da igual qué tipo de sindicatos sean decir que el gobierno

sí podemos coincidir con el planteamiento inicial de la propuesta realizada por el grupo podemos en relación a la situación

pública vasca sí que obviamente no coincidimos en alguna de otras posiciones que pueden estar defendiendo desde el grupo

concretas pero sí que entendemos que el objetivo tiene que ser reducir las

actual para cubrir las necesidades asistenciales existentes por eso uno de nuestros puntos se refiere a esta cuestión creemos que el objetivo tiene que

la plantilla actual y en la planificación

la consejera especialmente en la comparecencia para explicar las líneas estratégicas de su departamento al comienzo

sí que entendemos que hay que convocar un número suficiente de plazas para también bueno pues hacer frente a los retos que tenemos

estamos teniendo la ocasión también de escuchar a los sindicatos en la comisión de salud y en este sentido bueno pues todos los sindicatos

del departamento es claramente insuficiente para cubrir como decía las necesidades que tenemos en nuestros centros de salud en nuestras infraestructuras

a una población y a una demanda creciente sobre todo en la prestación de determinados servicios como puede ser la atención a las personas crónicas y qué no decir también de la necesidad también de mayores recursos para hacer frente a la situación del covid que está incidiendo de forma muy clara en la asistencia sanitaria y que está suponiendo una carga asistencial una sobrecarga sustancial importante

que ese número de plazas que inicialmente se ha ofertado

puestos de trabajo de futuras ope se pueda revisar y también bueno pues se tengan en cuenta las peticiones que de alguna forma se están haciendo desde

a esa situación porque este número de plazas es claramente insuficiente por otra parte también creemos que es necesario

procesos de gestión de la ope que permitan agilizar

aquí los procesos actualmente de convocatoria de una ope se extienden mucho tiempo y no voy a decir ya y voy a hacer un inciso para obviamente referirme a un capítulo

un punto claramente negro en la historia de las oposiciones

como todos recordaremos pero son las irregularidades oferta pública de empleo que bueno que dieron lugar también a dimisiones por parte de responsables del departamento de salud y

aparte de que se agilicen los procesos de gestión de las ofertas públicas de empleo futuras es necesario también dotar a una oferta pública de empleo visto lo visto de los mecanismos de transparencia absolutamente necesarios para que no haya ninguna sombra de duda de que se garantiza la imparcialidad la objetividad en este tipo de procesos públicos yo creo que también bueno pues conviene también

tuvimos ocasión de constituir un grupo de trabajo la pasada legislatura específicamente para analizar los procesos de las ofertas públicas de empleo de osakidetza que se atiendan algunas de esas

ofertas públicas de empleo que se convoquen en las futuras ope que se convoquen

nos hablaba y es algo que lo han repetido

y que permitan cubrir las necesidades con más rapidez y con mayor periodicidad que lo que supone organizar una ope con número importante de plazas que se puedan convocar vemos que también otro de los puntos importantes tiene que ser subsanar posibles deficiencias que puedan

temporal sabemos que también en este tipo de listas también hay problemas y en ese sentido sí que creemos que hay que

de contratación temporal por otra parte como nos decía la consejera en la contestación a la interpelación

con lo que señalaba la consejera de salud es identificar las plazas que puedan ser de difícil cobertura yo creo que esa es una cuestión también importante

instamos también a que se realice un estudio que trate de identificar estas plazas y poner soluciones

uno de los puntos que han suscrito en el acuerdo de transacción

obviamente queda claro que tienen que tener nuestros profesionales los equipos de protección adecuados y también estamos conociendo que

profesionales proporción de mascarillas

sí que es cierto que todavía existen algunos déficits en algunas situaciones concretas algunas diferencias como se nos decía también ayer

hospitalaria y en ese sentido yo creo que también se tiene que hacer un esfuerzo creemos que se tiene que hacer un esfuerzo por parte

y por otra parte creemos también que no podemos abandonar el tema específico y el ámbito de la conciliación y en ese sentido habrá que analizar las medidas actualmente existentes y las que se puedan adoptar para también facilitar la flexibilidad horaria bueno azkenean gure proposamena defendatuko dugu

muchas gracias señora presidenta la moción que

es consecuencia de la interpelación que se formuló el pasado treinta de octubre y en la que se formulaba una concreta pregunta que era qué medidas

en la sanidad pública vasca y nuestra enmienda lo que ha pretendido es precisamente responder de una forma ofrecer una respuesta clara sobre la hoja de ruta que tenemos marcada negociación plazas y presupuesto respecto a la negociación

las negociaciones con los sindicatos de la sanidad pública

que en cualquier caso tendrá que tener su reflejo también en una mejora del servicio público a la ciudadanía con respecto a las plazas

de oferta de empleo público y en cuanto a los presupuestos pues parece evidente pero no nos cansaremos de repetirlo existe el compromiso de presentar en este parlamento un proyecto de presupuestos que incorpore precisamente las medidas comprometidas para el refuerzo de nuestro sistema de salud

existe un compromiso claro tanto con el reforzamiento de nuestro sistema sanitario como con el propio diálogo social algo que los socialistas pensamos

porque como no puede ser de otra manera se imaginarán los socialistas siempre apostamos por el mantenimiento del diálogo constante en todos los sectores y el ámbito de la salud pública no va a ser una

que es el momento de la búsqueda de las soluciones más que el momento de la búsqueda de la confrontación en su iniciativa el grupo

de manera urgente la negociación con los sindicatos de la sanidad pública y en este sentido tal y como podrán recordar ya cuando la

nos presentó las líneas estratégicas del departamento nos trasladó que se había reunido con todos los agentes sociales que representan a los trabajadores y trabajadoras

pero también nos dijo que a partir de ese momento iban a comenzar con las negociaciones en la mesa sectorial y esto me parece importante destacarlo

también en ese momento y precisamente ese es en el momento en el que estamos hoy yo no me voy a perder en un debate que se ha planteado en

que es si el carácter de las reuniones que se tuvo con

sociales de los trabajadores eran meras reuniones de cortesía o no parece ser que quienes así lo han hecho público así lo entienden pero

y propuestas concretas pero dicho esto no voy a ahondar demasiado en el tema porque como les decía lo importante es que en el ámbito del diálogo en el marco del dialogo donde ya estamos es en el momento en el escenario de la convocatoria de mesa sectorial y yo creo que eso avala un compromiso claro con ese diálogo y ese marco negociación y sinceramente creemos que en el marco de la negociación con los sindicatos de la sanidad pública el objetivo debe ser lograr un acuerdo que en cualquier caso

a la ciudadanía y este apunte es importante porque más allá de las legítimas reivindicaciones laborales que evidentemente se pueden plantear el objetivo debe ir siempre enmarcado en esa mejora del servicio público a la ciudadanía algo que creo que todos los que estamos aquí sentados compartiremos

está empeñado también el gobierno vasco y por supuesto los grupos que apoyamos al gobierno vasco porque es evidente que la covid diecinueve

ha tensionado nuestro sistema sanitario como se ha dicho y es verdad pero creo que tenemos que

y mirar a nuestro entorno la covid diecinueve ha tensionando todos

sanitarios todos incluso los de los países comunidades que en algunas ocasiones se han querido poner de ejemplo o de espejo en el que mirarnos y esto es así por una cuestión lógica y yo lo he dicho muchas veces en esta tribuna

ordinaria de los sistemas sanitarios no estaba pensada para la gestión de una pandemia y eso ha hecho que a partir del mes de marzo todos los sistemas sanitarios tuvieran que ponerse las pilas para abordar esta problemática concreta y se han

se han adoptado decisiones por los profesionales y también se ha pedido a los ciudadanos que asuman esas medidas

una cuestión puntual que estaba alterando la realidad sustancial de toda la ciudadanía

sistema sanitario y eso nos plantea retos

y también ser lo suficientemente inteligentes para aprovechar la experiencia que hemos acumulado de la primera oleada

porque estamos en lo más inmediato sí pero también estamos en una apuesta general por el reforzamiento y la mejora de nuestro sistema de salud a través de la inversión en personal en nuevas infraestructuras en investigación y en procesos y yo por eso cuando les

de autocomplacencia me rebelo porque no es verdad en donde estamos es en autoexigencia autoexigencia para dimensionar perfectamente

de mejor abordar y también autoexigencia para abordarlo porque

en la iniciativa en el punto segundo en el pleno pasado

que allí dimos y tampoco en los compromisos que pusimos encima de la mesa que por cierto también se

en ese debate y me voy a centrar en la primera parte del punto segundo de su moción la referida a la equiparación a la medida de la ue en la partida destinada a la sanidad pública

es un ámbito comparativo es verdad pero la realidad señor hernández y usted lo conoce es que ninguna comunidad autónoma en españa cumple ese criterio y ni siquiera españa en su conjunto lo cumple quizá sea un ámbito en el que debamos avanzar todos pero lo cierto

el lugar de salida y de dónde venimos y por poner las cosas en su sitio en el de dónde venimos

en el que sin incorporar los gastos extraordinarios que han tenido que hacerse por la pandemia de la covid diecinueve ya se contemplaba una previsión de gasto para el departamento de salud de tres mil novecientos cuarenta y dos millónes de euros de los once mil setecientos cuarenta y cuatro millónes

venimos de unos presupuestos en constante crecimiento en el ámbito de la salud

del año pasado y vuelve a repetir sin contar los gastos extraordinarios

venimos de unos presupuestos que han puesto a euskadi a la cabeza de gasto sanitario por habitante en comparativa con el resto de las comunidades autónomas y quizá

algo que ver con los altos grados de valoración que nuestra ciudadanía da a nuestro sistema público de salud incluso en los momentos de gestión de la pandemia y ese es el escenario de partida no otro y yo creo que es importante dimensionar

sí claro todo es mejorable y esto no va a ser una excepción y la propia sailburu en su contestación a la interpelación indicó alguno de esos puntos en los que ya se está trabajando ejemplo en el ámbito de los recursos humanos consolidación y ampliación de plantillas se indicó que se está realizando un estudio para determinar el porcentaje de eventualidad que debe consolidarse como estructura algo que viene a responder por cierto al punto tres de la moción que

porque es verdad que existe un porcentaje de personal eventual que está realizando actividades y tareas que dan respuestas a necesidades organizativas de carácter permanente y estructural y eso hay que corregirlo y no son mis palabras son las de la sailburu el pasado día treinta

respecto al sistema de contratación se anunció la voluntad de encontrar fórmulas que permitan mejorar la calidad de la contratación y que se va a iniciar en la mesa sectorial un proceso de negociación y también se habló de medidas concretas en concurso de traslados salud laboral conciliación etcétera etcétera en este sentido dado que no ha sido posible llegar a un

una enmienda que como le digo aporta una respuesta clara a la hoja de ruta negociación plazas y presupuesto nada más y muchas gracias

señor hernández comenzaba usted la interpelación que dio pie a esta moción hablando de la huelga convocada por los sindicatos de osakidetza

que la misma tenía una razón de ser obvia y que había que darle respuesta desde el gobierno vasco así en crudo el razonamiento parece impecable aunque como en todo razonamiento hay que considerar las premisas en las que se basa algún sindicato

y eso nada tiene que ver con una movilización hecha al hilo

sino que a veces y usted lo sabe mejor que nadie en esta cámara

se posicionan políticamente lo que no voy a criticar aunque normalmente ese posicionamiento nada tiene que ver con la misión

y con la que tienen que ser tomados en cuenta a la hora de establecer negociaciones a veces

o sobre si hay que romper relaciones con el estado o cualquier otra cosa insisto que son legítimas pero que exigen un análisis a la hora del razonamiento lógico que usted hacía en su interpelación sobre la repuesta que hay que dar a una huelga convocada por los sindicatos

extrañas al realizarse en diferentes fechas en cada territorio aunque yo no voy a entrar a valorar la rareza de las mismas pues en principio valen igual que las demás

no han sido respondidas de un modo masivo por no decir que lo han sido de una manera relativamente escasa aunque siempre se puede decir

el paro de facultativos ha sido del nueve coma siete por ciento el de enfermería el siete coma dos y el de resto de categorías el nueve coma siete y esto en principio no habla de una convocatoria exitosa

entre que los convocados son muy profesionales y saben que esto no son los mejores momentos para convocar una huelga

es probable que la convocatoria fracasara lo que no obsta a que el gobierno atienda la llamada y no dude que la atenderá ya se lo dicho

mejor época para forzar a la administración sanitaria una negociación pues tanto responsables políticos gestores trabajadores se encuentran envueltos en una vorágine de gestión sanitaria

y en este sentido aunque es cierto que desde junio no se reunía la mesa sectorial por la situación que vivimos el pasado lunes estaba convocada otra que no se concretó

pero que se va a hacer el día veintiséis para reinstaurar una normalidad aunque esta sea precaria

recuerde cosas tan gruesas como el retraso de las propias elecciones autonómicas

al tiempo de todo esto el gobierno el programa del gobierno vasco habla de ampliar partida de personal facultativo plazas de enfermería interna residente y desburocratizar labor de personal médico y enfermería

entre el veinte y el veinticuatro modelos de selección garantizando la transparencia la justicia y la equidad

profesionales e incrementar dotaciones impulsar programas de formación específica para personal facultativo y de enfermería

promover un sistema de movilidad abierto y programa de conciliación corresponsable del personal

y todo ello viene a significar que hay elementos y voluntades suficientes para abordar y negociar acuerdos y todo eso los sindicatos lo sabían

a partir de ahí en su moción aparecen otras apreciaciones que voy a intentar desglosar por un lado

que la lista de espera no sea superior a cuarenta y ocho horas y algo más impreciso que esa

que aumente la calidad de la atención primaria aceptada sobre si hay que dedicar a la atención primaria el veinticinco el treinta o el cincuenta por ciento mire la verdad

pues supongo que dependerá de cada osi de las infraestructuras que operen en la misma de la tipología de población que atienda

sino porque ya lo hicimos extensamente la pasada semana con los compromisos adquiridos por el gobierno para con la atención primaria y que tanto nuestro grupo como el socialista

ustedes y bildu y el partido popular se abstuvieron luego nuestra propuesta

y aunque algo le conteste hace quince días que nos vemos aquí cada jueves y lo que te rondaré morena

casi el sueño porque es un asunto que tras analizarlo primero por encima porque es una cifra que se va diciendo de un sitio a otro terminó por subyugarme por lo extraño de las cifras

usted dijo que la comisión europea en su estudio de la salud señala que el estado español destinó en dos mil diecisiete un ocho coma nueve por ciento del pib a sanidad que la media de la unión europea ese mismo año era del nueve coma ocho y que en euskadi estaba cinco coma dos vale mire

cojo el ministerio la página web del ministerio de sanidad sobre gasto de sanidad en europa y dice que españa gasta el seis coma tres por ciento del pib lejos del ocho coma nueve

una publicación estadística el gasto por persona en andalucía era mil doscientos doce rioja mil cuatrocientos setenta y siete nafarroa mil seiscientos cincuenta y uno y euskadi mil ochocientos uno

sobre el pib es del cinco coma cuatro más lejos ya

o cada uno se refiere a algo diferente sin contrastar suficientemente

nos dijo que el dos mil diez se dedicó el cinco coma tres por ciento del pib a sanidad y el dos mil veinte el cuatro coma ocho y yo pensé de dónde saca el dato del dos mil veinte

vamos a tener que va a ser bastante menos del previsto el uno de enero ni sabe el gasto de sanidad que vamos a ejecutar que va a ser bastante más alto

como resumen si españa gasta el quince coma cuatro por ciento del presupuesto en sanidad

mientras euskadi el treinta y tres por ciento y mil ochocientos euros por persona

el ocho coma nueve por ciento del pib y euskadi el cinco coma dos miren

dedicó el cinco coma dos por ciento del pib al tema y aquello supuso un treinta y dos por ciento del presupuesto total del gobierno llegar por ejemplo al siete por ciento

que sería el cincuenta por ciento del presupuesto llegar al nueve coma ocho que demanda usted supondría ocho mil ciento veinte millónes o sea el sesenta y nueve por ciento del presupuesto

cada vez que pidan algo pongan abajo un suplemento de lo que cuesta para que lo valoremos más sencillamente y no esté yo

y para terminar este lío numérico le voy a dar la clave

que habla de los países de la unión europea pero en su primera página en su primera página

del gasto en salud y sabe lo que incluye todo el gasto en salud el público el privado seguros públicos seguros privados todo el gasto luego no son comparables el cinco coma dos por ciento de gasto público real

nueve coma ocho del estado español han creado una verdad

que todos repiten sin haber nadie contrastado alguien aquí señor hernández no está diciendo la verdad mientras tanto quizás sea mejor

con quién gasta más y apostemos por lo que señalamos el nuestra enmienda que señora garrido la presentamos tiene usted tanto trabajo

la nuestra no es otra propuesta que seguir creciendo evitar los recortes un año en que podía parecer inevitable que se hicieran

seguir avanzando y creciendo para seguir teniendo una mejor salud pública muy valorada pero siempre mejorable muchas gracias eskerrik asko tellería jauna

señoras señores parlamentarios la actual crisis sanitaria ha dejado en evidencia que osakidetza no es una de las mejores sanidades del mundo aquí en el país vasco

recursos hospitalarios sin medios suficientes para atender las demandas crecientes equipos directivos incapaces de prever lo que se les venía encima que además sin pudor se les enviaba a los trabajadores a primera línea apenas protegidos con bolsas de basuras y mascarillas reutilizadas

muchos años envueltos en ensoñaciones interesadas que han proyectado los sucesivos gobiernos esa obsesión por presentar lo vasco como lo mejor de lo mejor ocultando los graves problemas estructurales que ahora ya nadie puede esconder

no actuaciones a golpe de movilización sindical o de intereses partidistas de quien gestiona nuestro gobierno o

vemos cómo todo se plantea en términos de disputa de sindicatos contra todos de profesionales sanitarios contra los gestores de la oposición

y lo que necesitamos no es esto es transparencia pedagogía social estudios sesudos y un plan de futuro sí un plan y por supuesto

inicial propuesta por podemos creemos en la convivencia de dos sistemas de salud uno muy fuerte que en este caso sería el público y por otro lado otro privado

porque todo es sanidad la demanda de la sanidad es más que notable y además siempre creciente y creemos que hay trabajo de sobra para todos ni todo puede ser

ni todo puede ser privado y ustedes defienden abiertamente un modelo todo público que no podemos apoyar lamentándolo mucho sí estamos a favor de un estudio de las condiciones laborales y salariales de los profesionales de osakidetza

sí a reforzar nuestro sistema público de atención primaria por acciones concretas y no solo con palabras y buenas intenciones vacías y por supuesto sí a hacer autocrítica para corregir errores y avanzar

a esa convivencia de lo público con lo privado en cuanto a lo dicho por el señor rico que está tomando el gobierno junto con el apoyo de psoe ha hablado de la autoexigencia

positivo a tener en cuenta pero creo que se les olvida también un auto importante que es la autocrítica ya sabe que con la autocrítica se aprende de los errores muchas gracias

el señor tellería nuestra moción y la interpelación que hice

cuál es la respuesta cuál va a ser la respuesta del gobierno vasco a las demandas de los sindicatos planteadas

en esa huelga nos dice el señor tellería que aunque lo comprende y aunque el gobierno va a responder no es el mejor momento para abordar con calma la negociación

han tenido diez años una de las cuestiones que están reclamando precisamente es el convenio que regula sus condiciones laborales que lleva desde dos mil nueve

cuestiones que defendemos quienes estamos trayendo este conflicto al parlamento porque el conflicto no nos lo inventamos nosotros el conflicto existe

es que no es un problema coyuntural que esto no responde a lo que ha pasado ahora con la pandemia que lo agudiza obviamente lógicamente es un problema estructural es un problema de modelo de la sanidad pública con el que se ha encontrado que ha generado el gobierno vasco en la última

podemos discutir sobre las cifras necesarias en presupuestos para la sanidad pública desde luego los datos que nosotros

sindicales son perfectamente válidos porque la comparativa entre unión europea

responden a un mismo documento el mismo análisis que habrá

y por lo tanto la comparativa es válida otra cuestión es que se prefiera coger otro tipo de datos para nosotros eso tampoco

es que todos los representantes de las y los trabajadores de la sanidad pública nos están diciendo que hay escasez de recursos y cuando hablamos de millónes de euros

que el presupuesto del gobierno vasco cuando llega el próximo dieciocho diciembre vendrá el señor azpiazu

pero cuando quienes están trabajando en la sanidad pública y conocen las necesidades que existen no solo para sus condiciones de trabajo sino para dar el servicio de sanidad pública que hace falta ustedes están diciendo que faltan recursos y esa es la cuestión

y a la que el gobierno vasco no es que deba atender de acuerdo dice el señor tellería que van a atender pero es que llevamos diez años en los que no atienden estas reivindicaciones es una cuestión no es una cuestión

y a nosotros nos sigue pareciendo que se cuestiona la labor de los sindicatos y que seguramente detrás de eso está la explicación de esa discusión

señor tellería de una manera suave pero también ha vuelto a dejar como que detrás de determinadas huelgas usted ha mencionado las declaraciones de ela sobre un otoño caliente yo creo que ayer escuchamos perfectamente al sindicato médico de euskadi creo que al sindicato médico

estoy seguro que usted comparte conmigo eso y fueron muy claros

y explicaron perfectamente las reivindicaciones y coinciden con la

de sindicatos por eso es importante y es urgente que se sienten y negocien las cuestiones concretas comisiones obreras ayer también nos decía

no parece tampoco que en el orden del día vayan a estar las cuestiones que plantean no lo digo yo lo dijo él estaba usted allí en la comisión y además yo le pregunté

esta vez parece ser que no va a ser una reunión de cortesía va a ser para negociar yo conozco la negociación colectiva un poco en el ámbito privado

pues desde luego mal mal asunto

el gobierno vasco en la política de sanidad pública tiene que dar un giro importante para nosotros la cuestión de las privatizaciones es también muy importante yo sé que es un modelo

ocasión de intercambiar opiniones el primer día con la consejera

pero yo creo que el gobierno vasco tiene que dar respuesta a los sindicatos porque muchas de las cosas que están planteando son fundamentales llevan muchos años sin tener respuesta llevan muchos años diciéndonos que se encuentran con un muro

en la sanidad pública que es una cosa fundamental nos dicen que se encuentran con un muro y no es solo aquellos sindicatos que ustedes consideran que tienen un plan contra el gobierno

presidenta bueno señor tellería como sabe que las enmiendas a las mociones se reparten no

grapada en el paquete inicial pero bueno lo he subsanado señor tellería y como he visto que ha salido en el turno de enmendantes pues ya supuse que habían presentado enmiendas y aquí la tengo o sea que la he leído

con atención quiero decir que tampoco pensaba que podía haber muchas pues muchas sorpresas y no me dijo la verdad ninguna porque más bien

continuista y no con la ambición necesaria lo que se plasma en la enmienda suscrita entre euzko alderdi jeltzalea y el partido socialista de euskadi para hacer frente a

es un texto insuficiente y por puntualizar simplemente al señor hernández ya le he dicho que en algunas cuestiones podemos coincidir pero en otras estamos en las antípodas no podemos coincidir con ustedes cuando hablan claramente de que

nosotros sí que creemos en esa fórmula de colaboración y más en escenarios complicados como en el que estamos viviendo en que no se puede escatimar

están apelando continuamente a que haya más recursos en la sanidad pública y a la vez no quieran una colaboración con la sanidad privada vía convenio vía acuerdos específicos como existen muchos que se pueda

esa colaboración y contribuir por ejemplo a que disminuyan las listas de espera

ese planteamiento sin perjuicio de que obviamente

y en eso sí que podemos coincidir que la sanidad pública se tiene que dotar de mayores recursos y de mayores efectivos y de mayores profesionales y que hay un déficit pero no de ahora de hace mucho tiempo

dijimos que era absolutamente insuficiente y acabo también de decir que las

que por cierto es el número al que hace referencia en su enmienda el pnv y el partido socialista de euskadi también lo consideramos

en decir que no se colabore y que no se concierte con la sanidad privada que como digo que también se puede hacer un trabajo

se trata de dar un servicio de calidad a los ciudadanos y sobre todo en una situación de necesidad

actualmente estamos padeciendo en cualquier caso defenderemos nuestra

presidenta yo voy a agradecer el tono en el que hemos desarrollado este debate eso me parece importante porque no es el mismo tono con el que hemos desarrollado otros en el ámbito sanitario me parece un avance muy importante y bastante considerable pero dicho esto es verdad que el tono ha sido

ha empleado una dialéctica con la que yo no estoy de acuerdo una dialéctica en muchos casos de confrontación de unos de otros de lo que unos defienden

la señora ubera no una parte de la cámara otra parte de la cámara y esto me recuerda a algo que un parlamentario socialista que estuvo muchos años aquí jesús loza cuando hablaba

de qué parte estaba en un conflicto el siempre respondía yo soy prosolución y efectivamente esa es la respuesta

objetivo ha habido una huelga se podrá estar de acuerdo o no con lo que se plantee pero ha habido una huelga hay una predisposición por parte del gobierno para sentarse a dialogar

a dialogar y busquemos una solución y eso es lo que se ha planteado aquí por parte del gobierno y lo vuelvo a decir desde la primera comparecencia

en la que estábamos todos los portavoces de salud y se dijo y dijo me he reunido con todos los representantes

y a partir de ahora empezaremos a negociar en mesa sectorial está recogido en el diario de sesiones no hubo que esperar

esa mano tendida a llevarlo a la mesa sectorial

la señora consejera y nos lo trasladó era una voluntad de inicio

yo no voy a entrar en esa confrontación dialéctica

con unos con otros yo creo que todos los que estamos aquí estamos y además es una declaración que hago con convencimiento estamos por la mejora

ese es el objetivo y creo que si nos ponemos ese

y la pena será que se llegue a un acuerdo entre sindicatos y gobierno y aquí seamos incapaces

y eso nos tendrá que hacer reflexionar y eso nos tendrá que hacer

si hay otra cosa que tampoco me ha gustado y señora ubera se lo digo directamente nos dice en la segunda intervención yo no voy a cuestionar la voluntad

no es verdad es que no es verdad lo acabo de decir

es que hay una mesa sectorial convocada convocada

y evidentemente autocomplacencia yo se lo digo autoexigencia

nos lleva a tener que dimensionar realmente de dónde venimos

de dónde estamos viniendo hacia el destino que queremos coger porque ustedes dicen no esto no esto no lo ha causado la pandemia esto viene

háblese pero también seamos realistas cojamos los datos se lo he dicho antes la inversión que se hace en los presupuestos de nuestra comunidad autónoma de salud pública daba el dato el señor tellería treinta y tres por ciento en el año

dos mil diecinueve y eso sin contar el gasto de la covid diecinueve sin contar el gasto de la covid

nueve coma ocho del pib pero claro

es que durante diez años no ha reinado el caos en la salud pública no es verdad es que incluso la ciudadanía ha valorado positivamente la gestión

por lo tanto yo creo que nos tenemos que poner aquí y voy a terminar con esto la bandera de la prosolución de la búsqueda de la solución por lo menos nosotros estamos en eso

la moción de hoy es exactamente la misma que la de la pasada semana exactamente la misma solo que la

de mejora de la atención primaria porque lo pedía la ciudadanía y la de usted es menos hiperbórica porque

pero es la única diferencia también le reitero que las medidas para esa mejora ya estaban en la enmienda aprobada la pasada semana le recuerdo que ustedes se abstuvieron aunque además en esta vez le hemos añadido dos cosas por un lado

y que continúen las conversaciones y negociaciones con los sindicatos que nosotros estamos por que haya esas negociaciones

le estamos dando vueltas a la noria nos vemos en los mismos lugares en el mismo espacio físico también le voy a recordar

estamos dispuestos a transaccionar tenemos nuestra mejor disposición pero transaccionar

y cuando yo vea una propuesta de ceder y de negociar estoy dispuesto pero también lo que quiero es una actitud

tiene que ser algo más en continuo pero nuestra disposición es total y volvamos a los números porque

lo que marca los titulares que todo el mundo suelta y que eso lleva luego a tomar determinadas conclusiones mire ustedes

al año por persona navarra mil seiscientos cincuenta y cinco y rioja mil cuatrocientos setenta y siete aquí

que era un cinco coma uno por ciento más que el anterior el peso relativo del departamento de salud creció un tres coma siete somos el gasto por persona en la comunidad que más gasta en el estado y desde dos mil trece no ha parado de crecer vale

queda ahí y todo el mundo lo repite es como un amigo mío que una vez me dijo que el papel albal no se puede envolver por la parte brillante porque tiene veneno y le dije y eso quién te ha dicho y dice el whatsapp pues esto lo mismo alguien ha mandado un whatsapp y se acabó

el cinco coma dos por ciento de euskadi es el gasto real público sobre el pib en la ocde para desgracia nuestra no sale el dato de euskadi sale por estados por estados

vale luego el cinco coma dos por ciento está cogido de la realidad y el de la ocde con el cálculo del gasto que yo le he dicho es el único

usted puede creer que la media de gasto en europa en salud per cápita

yo no si es en gasto en salud pública en ese mismo estudio

y sabe lo que gastó por persona en salud

y el diecisiete por ciento del pib en salud eso es

pues mire si es en salud pública yo no me lo creo pero todo tiene su pequeña revuelta porque

y por ejemplo dice que uno de los países europeos que más gasta

pero en otro apartado que habla de enfermedades psiquiátricas hace otra estadística que es el porcentaje

la media europea es de tres coma uno la de dinamarca es once coma uno a veces el dinero no da la felicidad muchas gracias eskerrik asko

la demencia es un término genérico que se utiliza para referirse a varias enfermedades

enfermedades progresivas y que acarrean un deterioro progresivo en la persona que lo sufre afectan a la memoria otras capacidades cognitivas y el comportamiento

capacidad de la persona para llevar a cabo actividades cotidianas

que llega a representar el sesenta y el setenta por ciento de los casos también es cierto que con el término

de demencias más bien entonces por lo tanto podemos decir que

estamos haciendo referencia a una condición de la salud que abarca también como decía las demencias

el alzhéimer es una patología neurodegenerativa que se manifiesta a través del deterioro cognitivo y

y de otras capacidades mentales a medida que se van muriendo las células nerviosas y se atrofian distintas partes del cerebro

al final va sufriendo un deterioro progresivo que le lleva

los cuidados y obviamente la capacidad de la persona en cuestión que sufre esta enfermedad puede durar en vida viviendo con esta enfermedad diez años por lo tanto tenemos que decir claramente que el abordaje

constituye una clara prioridad sanitaria y en ese sentido la coalición partido popular ciudadanos reclama un plan

del país vasco que aborde cuestiones como su dimensión

los sectores de la población que se puedan ver afectados que se ven de hecho afectados que no solo son las personas que sufren esta patología sino el entorno familiar y las familias que cuidan

podemos decir que en la comunidad autónoma afecta aproximadamente a más del ocho por ciento de la población que tiene más de sesenta y cinco años estamos hablando de casi

y que además esta enfermedad va a seguir teniendo un fuerte impacto en la salud porque

a lo que hay que añadir el triple de personas personas cuidadoras que se ven afectadas diariamente también por el impacto

que ocasiona esta enfermedad por eso decíamos que es necesario un plan integral que aborde esta patología un plan con rigor y que desde luego atenúe las consecuencias de esta enfermedad todos conocemos

del plan mundial de acción mundial para la respuesta de salud pública a la demencia dos mil diecisiete dos mil veinticinco con unas líneas estratégicas de actuación

la demencia como prioridad de salud pública la sensibilización y adaptación a la demencia reducción del riesgo de demencia

investigación e innovación también conocemos el plan nacional del alzhéimer y otras demencias dos mil diecinueve dos mil veinte se aprobó el año pasado y es un plan integral

y un problema social y sanitario de primer orden

esta enfermedad y ello conlleva la necesidad imperiosa de poner en marcha actuaciones para ofertar respuestas específicas integrales

a las personas que cuidan a las personas que tienen esta enfermedad hay que recordar también la especial situación de vulnerabilidad de las personas afectadas que haya que buscar

como decía la pasada legislatura ya se aprobó un acuerdo a instancias del grupo popular un acuerdo por unanimidad

de enfermedades neurodegenerativas y neuromusculares en euskadi se elaborara un plan integral de alzhéimer para la comunidad autónoma del país vasco

la legislatura acabó y no tuvimos en noticias de dicho plan

y hemos considerado oportuno volver a traer este tema por su importancia

un plan integral de respuesta a las personas que tienen alzhéimer

por su dimensión por las personas que afecta y que en un futuro van a ser más como decía en euskadi tengo que decir que hemos alcanzado finalmente

al gobierno yo agradezco a los portavoces y al señor aiartza con el que he negociado este asunto

un acuerdo que yo creo que es bueno y esperar también que si no

a una cuestión específica de bildu que hacía referencia a modificar

plan integral de demencias pero como le he dicho al final con el término alzhéimer también estamos englobando las demencias y es el término que se utiliza ya le he dicho

a nivel europeo cómo se denomina se denomina claramente

y también el plan que tenemos aquí

hemos llegado a dicho acuerdo yo sé que se empezaron a realizar algunas actuaciones la pasada legislatura así me lo ha constatado el departamento y

se empezó un camino pero que dicho camino no se pudo culminar por el fin de la legislatura y también por la incidencia también

de la pandemia pero en ese sentido bueno pues instamos al gobierno vasco a que bueno a la mayor brevedad posible se pueda elaborar

que se cuente con las personas que trabajan en el sector con los diferentes agentes que se remita también al parlamento vasco porque una cosa es tener un plan pero lo que tenemos que saber luego es cómo ese plan se ejecuta y que se pueda dar cuenta

evaluar ese plan anualmente en este parlamento y también que si de dicho plan se deriva la necesidad y de la propia estrategia la necesidad

que se haga como digo yo creo que es un acuerdo positivo la pasada legislatura fue posible llegar a un acuerdo por unanimidad y espero que esta vez también sea posible porque yo creo que los grupos también enmendantes

en que se haga este plan y esperemos señor lehendakari que tengamos este plan en el parlamento a la mayor brevedad posible para dar solución
y tratar de paliar el impacto de una enfermedad que afecta a muchas personas en euskadi besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko

buenos días les confieso que esperaba la versión del parlamento vasco del día de la marmota pero el partido popular me ha despertado en un nuevo día eso sí que promete reunirse y volver a producirse en el tiempo llega a un acuerdo

y hoy lo hace para ahondar un poco más en la singularidad vasca aunque estamos hablando de una enfermedad que es igual de trágica aquí que en cualquier otro sitio vaya por delante que sé que la realidad de las personas con alzeimer como las de cualquiera que sufra una

para aquellas personas que les cuidan generalmente del entorno más próximo y con escasa o nula preparación para realizar un trabajo muy duro física y mentalmente y vaya también por delante que sabemos que existen recursos públicos y privados

de quienes padecen estas enfermedades ya sea directa o indirectamente aunque aún hoy sigue habiendo un número importante de pacientes y familias a los que esas ayudas no llegan que sufren día a día los rigores de patologías muy duras y crueles pero no acabamos de entender el enfoque local que se quiere dar al abordaje integral del alzhéimer de las demencias

también con los recursos sociales bastantes y diversos pero el plan ya existe existe un plan nacional de alzhéimer para una atención especial organizada coordinada

el marco teórico ya está detallado también apuntadas las necesidades de los pacientes y sus familias así como actuaciones concretas para ofrecerles la mejor

también para sensibilizar a la población sana y avanzar en los ámbitos de la investigación y de la innovación un plan al que han contribuido instituciones agentes entidades especialistas y personas vinculadas a los servicios sociales y al mundo asociativo de toda españa salvo del país vasco al menos yo no he conseguido encontrar ni una sola entre las colaboradoras a nivel del plan general de alzhéimer que sea vasca y estoy convencida de que los problemas de las personas con alzhéimer son muy parecidos aquí en burgos o en huelva

la angustia de los familiares la carencia de apoyo externo cada paso atrás propio del proceso degenerativo aquí y allá

eso sí es cierto que para su implantación en euskadi es preciso coordinar a los diversos agentes que trabajan en el país vasco concretar los recursos las personas a las que irán dirigidas las diferentes acciones en definitiva vox apoyará cualquier acción tendente a materializar el plan nacional en euskadi a coordinar perdón a todos los servicios disponibles en el país vasco para las personas con alzhéimer o con cualquier otra enfermedad

apoyar la elaboración de un plan vasco que consideramos innecesario y una auténtica pérdida de tiempo algo que los pacientes y familiares no tienen tiempo

trágica en muchos casos se ha convertido en una elección real debemos garantizar vidas dignas que merezcan la pena ser vividas para todas las personas y para ello tenemos que buscar fórmulas innovadoras

y las medidas para garantizar la salud física pero también mental

puede resultar difícil pero sin duda es algo indispensable imprescindible al menos para nosotras

yo no voy a ahondar mucho en esta cuestión porque venimos de un punto de encuentro de todos los grupos en esta cámara en la pasada legislatura

y la sensibilidad que despierta en todos nosotros por la crueldad del impacto de esta

entre los nuestros y precisamente esa sensibilidad ha facilitado el acuerdo

al que le agradezco y entiendo aunque ahora

me queda la duda de que hará eh bildu que recogerá

muy importante de esta cámara no sé si votarán o sea le estoy preguntando directamente

como acabo de decir hace ni tan solo un año el tres de diciembre de dos mil diecinueve todos los grupos

que venía a solicitar al gobierno vasco la elaboración y puesta en marcha

euskadi de un plan integral de alzhéimer para la comunidad autónoma

así como que para ello contarán con la participación de los agentes que trabajan en este ámbito y que anualmente se remitiera al parlamento la evolución y el grado del cumplimiento

que fuesen precisos para proporcionar una atención integral en los diversos ámbitos y como es lógico resumiendo mucho los socialistas estábamos de acuerdo con esto

y seguimos estando de acuerdo hoy que se plantea en el parlamento no hay mucho más que decir

nacionalistas vascos nos comprometíamos con este acuerdo y se recoge también en la enmienda transaccional ese compromiso con mantener el impulso

plan de atención de alzhéimer dentro de la estrategia para la atención de las enfermedades neurodegenerativas y neuromusculares

a la participación de agentes la dación de cuentas y las adecuaciones y desarrollos normativos necesarios conforme a lo establecido en el propio acuerdo de la comisión es algo en lo que el gobierno vasco se puso a trabajar ya desde la pasada legislatura

a la señora garrido en febrero y es algo que el actual gobierno ha retomado

y de eso ya se ha informado en esta cámara mediante respuestas dos respuestas a la propia señora

por lo tanto se trata de una cuestión que compartimos que es necesaria abordar y que este gobierno va a llevar a cabo dicho esto hombre yo sí creo que es bastante razonable entender que en el proceso de elaboración de una estrategia que incluye un plan como este en el que además se ha establecido como uno de los compromisos recogidos en el propio acuerdo el contraste con los diferentes agentes llamados a aportar pues que la incidencia del covid diecinueve haya

no una situación que hubiera sido perfectamente subsanable yo creo que es razonable y que en ese caso en lo que estamos ahora
es en esa fase de borrador que ya se le ha trasladado recoger todas esas aportaciones nada más y muchas gracias eskerrik asko rico jauna

realmente breve pero es una cuestión tremendamente importante esta para nosotros las enfermedades neurodegenerativas y las enfermedades neuromusculares

un motivo de preocupación para este gobierno sin duda gran número de enfermedades y con diferentes

dentro de las denominadas incluso enfermedades raras de baja prevalencia

con actualmente mucha o muy alta prevalencia y con desarrollaba la señora garrido también una idea la previsión a futuro no nuestro incremento el incremento progresivo de la esperanza de vida una excelente noticia

exponencial de la frecuencia de estas enfermedades y de su problemática sus manifestaciones también son muy heterogéneas en cuanto a sus manifestaciones clínicas y alteraciones patológicas y moleculares pero a pesar de todas estas aparentes diferencias tiene un factor común

en esta estrategia tienen como denominador común que son crónicas progresivas e incurables y se caracterizan

o del sistema nervioso periférico esto es la neurodegeneración

determina el deterioro paulatino de funciones neurológicas y el incremento de la discapacidad física y o cognitiva de los afectados y afectadas discapacidad creciente esa discapacidad y menoscaba la calidad de vida de las personas afectadas

al ámbito familiar y también al social por los elevados costes que genera en lo referido a la prevención una gran mayoría de las enfermedades incluidas en esta estrategia siguen sin poder

tratamiento que ralentice significativamente la discapacidad que provocan en el ámbito del diagnóstico además la posibilidad de hacer el diagnóstico temprano o presintomático

imposible o muy difícil en la práctica clínica habitual en definitiva la frecuencia la gravedad y la trascendencia personal familiar sanitaria y social de estas enfermedades plantean una necesidad la necesidad de un abordaje multisectorial y coordinado sanitario

y a las personas cuidadoras y siempre promocionando la autonomía de pacientes

salud del gobierno vasco es la respuesta a esta necesidad es la herramienta que tenemos para responder a uno de los grandes desafíos de nuestro sistema sanitario en las próximas décadas

nos parecía a este grupo parlamentario oportuno volver a traer esta iniciativa como ha hecho la señora garrido que si bien

poco menos de un año pues tenía altísimo sentido nosotros en su día también o recordando aquellas razones que argumentábamos

enfermedades también desarrollamos otra idea

neuromusculares con ese factor común del que hablaba antes y una tercera idea no la atención integral personas enfermas familias agentes personas cuidadoras

nos alegramos mucho en diciembre del diecinueve por la unanimidad y como decía el señor rico yo también espero que hoy exista esa unanimidad en lo específico o

creo que hay que destacar el reconocimiento que en ese acuerdo se realiza del trabajo del departamento de salud impulsamos le décimos que siga con las actuaciones encaminadas a cumplir con esos objetivos reconocemos las dificultades

en este reto el departamento porque todos somos conocedores de esas dificultades y también las entendemos

en lo referido fundamentalmente al punto dos del acuerdo original

no la posibilidad sino la necesidad de participación de los agentes implicados en esta estrategia

la pandemia ha complicado muchísimo esta cuestión por eso por eso nos parece fundamental además adquirir que es lo que hoy también adquirimos o instamos a adquirir al departamento un nuevo compromiso que es adaptándose a esta realidad a la realidad actual

ese tiempo que se ha cedido con motivo de la pandemia no perdido cedido se ha cedido por cuestiones perfectamente

conocidas entonces sabemos que el departamento va a recuperar tiempo solo me queda agradecer a la señora garrido su disponibilidad a la negociación y como decía también

si se me permite al resto de grupos a apoyar el texto

legislatura nosotros tampoco presentamos en aquella ocasión enmienda a la iniciativa

en aquel momento votamos a favor dijimos que estábamos de acuerdo y además dijimos que nos alegrábamos de ese acuerdo

oportuna por eso no hemos hecho enmienda nos parecía bien porque efectivamente no se ha acabado de implementar aquel acuerdo parlamentario y por lo tanto

es verdad que el gobierno empezó el trabajo para implementar aquel acuerdo y por lo tanto pues con la transacción a la que han llegado

vamos a votar a favor también he de decir y me voy a referir a la enmienda de a la totalidad de la señora garde porque

cosas interesantes que podían haber estado en este acuerdo de hoy yo desconozco las negociaciones porque como no hemos hecho enmiendas

siempre nos parece bueno yo sé que al gobierno se lo va a parecer y menos en esta situación pero nos parece bueno sobre todo

legislatura me parece que seis meses tampoco es

demasiado estrecho y luego pues nos plantea

redenominación cambiar el nombre al plan

que los argumentos que dan en la propia enmienda y en la explicación

en este grupo pero bueno yo creo que esa era también una aportación interesante

el impacto de la pandemia en este momento sobre esta cuestión pues también es más que evidente

al gobierno a que adapte el plan también a la realidad

una transacción aún mejor y nosotros la hubiéramos votado de mejor agrado no se va a votar la enmienda de eh bildu la hubiéramos votado también pero nosotros

estamos de acuerdo la única con la que no estamos de acuerdo es con

un debate como este para otro tipo de planteamientos que creo que no vienen al caso

porque como ven no estamos aquí solo para generar conflicto como a veces se nos dice si estamos de acuerdo con las cosas las apoyamos eskerrik asko

ya sé señora martínez que usted es nueva en esta cámara pero le puedo decir que en los años que llevo de parlamentaria se ha llegado al acuerdo

instado al gobierno vasco otros planes los ha elaborado el propio gobierno vasco y le aseguro que han sido muy necesarios para los colectivos a los que iban dirigidos

una estrategia de atención primaria que sí la hemos criticado pero ahí está una estrategia para el suicidio un plan para las caídas un plan para la atención

un plan para el desarrollo de la genética un plan de salud que acaba además ahora su vigencia el plan dos mil trece dos mil veinte en el que tuvimos ocasión de participar todos los grupos en el año dos mil trece y que tendremos ocasión de participar también cuando se remita el nuevo plan de salud para

como este plan este plan ha sido elaborado con las asociaciones dígale usted a las asociaciones del alzhéimer en euskadi que no es necesario un plan para el alzhéimer en euskadi

por que hay planes europeos no hay planes en españa por que hay planes en españa no podemos las comunidades autónomas desde el ejercicio leal

realizar planes para el abordaje de patologías que tienen una incidencia

como es la comunidad autónoma del país vasco en donde usted sabe muy bien como todos los parlamentarios en esta cámara

importante en la población yo le hablaba de unas cifras de un ocho por ciento pero le hablaba de que la previsión en los años siguientes es que incrementen las personas que puedan ser afectadas por esta enfermedad este texto como le digo ha sido consensuado con las asociaciones del alzhéimer de la comunidad autónoma del país vasco por lo tanto es el texto

ya trajo la pasada legislatura que se aprobó por unanimidad y yo lamento que esta vez no sea posible ese acuerdo con bildu porque la vez anterior y se reproduce el mismo acuerdo fue posible lo del plazo no lo poníamos la vez anterior creo que ya

una vez iniciada esta nueva legislatura y una vez que ya están los trabajos en marcha y que hay un borrador como se le ha respondido en la contestación a su pregunta pues hombre si no llega la estrategia de enfermedades

prudente pues tenemos también otros mecanismos para preguntar y hacer control a este gobierno en relación al retraso de este plan pero vamos a confiar también en que esta vez pues

a la mayor brevedad posible el año pasado como digo bildu se sumó a este acuerdo

yo creo que se puede hacer un esfuerzo para sacar además un texto que es el mismo yo ya le he dicho el tema de poner el plazo bueno pues se podía haber puesto pero creo que no es una cuestión

tan importante como usted lo ha reflejado en su intervención y luego sí que es una cuestión en la que no coincidíamos

redenominación del plan creemos que el plan se debe de llamar

ese título se corresponde con la realidad y se adecúa a lo que se quiere regular bueno yo sí que quiero bueno pues dar las gracias al señor rico y al señor aiartza por su disponibilidad

al margen de que haya dos partidos que en este momento conforman el gobierno vasco y que tengan mayoría es bueno yo creo que también aquí resaltarlo cuando se hace un esfuerzo por ensanchar

pues es positivo que los acuerdos salgan con el mayor aval posible de apoyo en esta cámara y en ese sentido pues que bildu

puesto que hace apenas un año votó a favor besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido andrea mistoak hitza hartu nahi du

alfredo rodriguez antigüedad gurutzetako ospitaleko

en base a prueba y error cambiemos para mejor nuestras decisiones

para que situaciones graves como las vividas en muchas residencias tales como personas aisladas viviendo y muriendo en soledad no vuelvan a ocurrir

gabeko neurriekin akatsa izan da que muchas de ellas continúen cerradas a cal y canto es un error

encerrar de forma prolongada a una persona con demencia o con alzhéimer es que no se puede

romper de un día para otro las rutinas que le sustentan y que contienen a la enfermedad

es que ni se menciona la pandemia no somos conscientes aún de que el colectivo del que estamos hablando hoy

han sido de los más perjudicados en la pandemia como para que el plan se adecúe y recoja esto solo habláis de pandemia para justificar los retrasos es que yo eso sí que no lo entiendo eta berrizendatzeaz galdetu didazue bada

eta ez duzu nahi izan gero diozu es que bildu va a apoyar o no va a apoyar o se va a quedar fuera o ez dakit eta bueno sin más

la costumbre me ha hecho venir hasta aquí yo quiero agradecer a los que han manifestado que van a votar a favor

de esta enmienda bildu no nos ha aclarado si se va a abstener o va a votar a favor

no sé si va a votar a favor o se abstendrá eso es lo que vemos cuando nos quiere mantener

y planteen el voto a favor para algo que hace un año menos de un año

la unanimidad de todos a mí no me parece justificable que ahora esa unanimidad no sea posible y luego hombre señora garde plantear aquí

ha tenido consecuencias sobre cualquier tipo de personas con una serie de patologías

usted cree de verdad que esos mismos agentes que van a ser llamados para completar este borrador no lo han visto porque usted ha hablado de una serie de personas que precisamente pertenecen a esos sectores

directo con esta serie de patologías hombre confíe un poquito de verdad que no lo hacemos para fastidiar a eh bildu

confíe en que cuando se aborda una cuestión una estrategia como esta

pueden acabar completando esa estrategia por lo tanto yo simplemente le pido que eh bildu

hace menos de un año y agradezco la transacción con partido popular
y el apoyo del resto de los grupos nada más y muchas gracias eskerrik asko rico jauna

gracias señora presidenta consejeros señorías buenos días de nuevo

la obra que nos ha enseñado y la verdad que sí que es cierto que hay que animarle no desde luego no con crisis como esta pero bueno a que siga desde luego

con la pintura con el dibujo pero bueno como tantos otros con tantas

votaremos a favor de la iniciativa que se nos presenta de la enmienda de transacción desde luego para nosotros cualquier paso que se dé pues será positivo y en la referencia

de los artistas de la gente de la cultura pues el hecho de ver acuerdos y de ver que puede haber esfuerzos en un sentido determinado

yo creo señor estarrona que la clave efectivamente usted toca varios puntos en su acuerdo pero la clave está en los próximos presupuestos también los próximos presupuestos

fundamentalmente de promoción de la cultura de patrimonio histórico artístico pero también de otros que pueden vincularse al desarrollo económico o incluso a la etb

el esfuerzo de reactivar la creación cultural de reactivar el arte

está claro que en los presupuestos en sus partidas está la clave de esa recuperación y del apoyo al sector ahora en dos mil veintiuno que va a ser esencial en relación

ese salir de la crisis en la medida de posible y quien pueda además porque algunos es posible que se queden por el camino por eso nuestra enmienda de totalidad estaba recogiendo esa preocupación

la cultura como usted lo ha dicho nosotros hablábamos de especial atención bien esencial

se reconoce lo que es nosotros queríamos que

las medidas que garanticen y refuercen los programas económicos de apoyo a los distintos sectores

el acceso a la cultura y en ese sentido pues respetando también el equilibrio territorial en colaboración con los diferentes actores artísticos y culturales y asociaciones o sea nosotros poníamos el acento en el esfuerzo que presupuestariamente se debe de hacer pues para superar

el hecho de cómo se ha gestionado y que en estos presupuestos con programas claros de apoyo

el esfuerzo de la política cultural de cara a ese apoyo y superar

lo que estamos padeciendo por ello también nosotros hacíamos una reflexión hacemos una reflexión ahora al hilo de esa enmienda y de este debate porque es necesario yo creo que

modificar los instrumentos que hoy existen de promoción

estar vigente pues habrá que verlo y analizarlo pero sobre todo también

de la cultura dos mil diecinueve dos mil veintidós es un elemento fundamental dos mil diecinueve dos mil veintidós y en la mitad de o al principio de esa andadura un inicio de esa andadura se ha visto ese plan

por este mazazo por este mazazo y yo creo que hay que referirse y hay que ir al plan

exponía el gobierno vasco la pasada legislatura que va a caballo entre la legislatura once y la doce

hablaba ese plan por eso mismo eso tiene que ir conectado con las ayudas y con el esfuerzo

de cara al mundo de la creación al mundo artístico o al mundo bueno del arte y de la cultura reflexionar y actuar sobre esas cuestiones que habla el propio plan sobre esas cuestiones de las que habla los objetivos las características y la cultura en ese plan al mencionar que el plan es

está claro el plan hay que modificarlo hay que reestructurarlo de cara al futuro porque este mazazo ha influido ya en la línea de flotación de lo que es cualquier estructura estratégica organizativa y en este caso la de la cultura en lo estratégico en los objetivos del informe en el aspecto estratégico

el primer objetivo del presente informe es definir las líneas principales de las políticas culturales para los próximos cuatro años y así garantizar su coherencia y continuidad pues esas líneas se han alterado gravemente se han alterado gravemente por la crisis que están padeciendo artistas y creadores

eso lo tenemos que repasar y el gobierno lo tiene que hacer yo espero

a la vista de esta iniciativa que lo pueda hacer también porque es el elemento fundamental el plan

vasco de cultura dos mil diecinueve dos mil veintidós está alterado gravemente por un factor

es muy grave y las características de ese plan respondiendo además a las características de ese plan

la cultura debe ser flexible y abierto para adaptarse a las nuevas situaciones y desafíos

tenemos que modificar ese plan decía que tenía que ser factible porque

en relación de dónde están las necesidades dónde la crisis que ha afectado a esos creadores a esos artistas a esos factores culturales no pues ahí está por eso tiene que ser factible y

prospectivos el plan era un plan a caballo entre la once legislatura y la doce

el gran mazazo a la cultura y a la creación se ha dado ahora en esa prospección hacia la andadura de esta legislatura doce

económicas en relación con la recuperación y hay una cosa fundamental para acabar en relación

la primera página después de la estrategia y de los objetivos y de las características en la cultura como cuestión social está bien claro que

es una cuestión social es una crisis social que afecta a la cultura o sea que en ese sentido el plan se debe

ha afectado a muchos profesionales no solamente estrictamente a artistas no solamente estrictamente a creadores o a actores culturales estrictamente como lo entendemos sino a una serie de empresas

y en ese sentido es un sector en plena transformación el cultural decía el plan pues ahora más que nunca

por eso este plan yo le aconsejo también que se relea

se haga un planteamiento en relación con sus propios postulados pues para recuperar algunas cuestiones para finalizar lo cierto es que es

no estamos hablando de teatro es dramática las situaciones de mucha gente de la cultura

de tantas iniciativas de espectáculos de conciertos de actuaciones de exposiciones de festivales

actores culturales sino una serie de profesionales de muchas características tenemos desde luego que solidarizarnos con el mundo de la cultura en el peor momento en el peor momento que han pasado desde decenas

insistimos e instamos al gobierno de una manera verbal pero aprovechando

son el instrumento esencial para esa recuperación o cuando menos

nos ha acompañado estos meses y sin ella la crisis hubiera sido mucho peor por el papel que cumple la cultura en nuestra sociedad desde elkarrekin podemos creemos que la cultura es un bien esencial y un derecho en marzo

de las últimas en recuperarse la crisis causada por la pandemia del covid diecinueve ha tenido repercusiones devastadoras en la industria creativa y cultural que después

el año pasado volvía a levantar la cabeza y lo que parecía ser el inicio de una recuperación se ha quedado truncado con la llegada del coronavirus

la segunda ola del coronavirus está golpeando con fuerza a la sociedad la incertidumbre sobre el futuro del sector cultural es incluso peor que cuando se declaró la pandemia a día doy cuando ha pasado la época estival y las representaciones se han agotado miles de creadores y trabajadores del sector cultural han perdido

es de los más innovadores emprendedores y resilientes pero para poder seguir creando produciendo obras que tanto necesita esta sociedad es especialmente durante esta crisis es imprescindible que las instituciones asuman su responsabilidad política como garantes del derecho de la cultura

a nadie se nos escapa que detrás de la creación artística hay mucho tiempo invertido hay trabajo de semanas meses o años trabajo de semanas meses o años son necesarios para sacar adelante una representación teatral un álbum musical una obra de danza o una representación gráfica

infinidad de artistas se han quedado sin poder

que hacen inviables las mayorías de los espectáculos el sector audiovisual también está muy afectado por esta crisis y esta crisis ha acelerado enormemente los tiempos de transformación digital que ha acentuado los problemas de concentración monopolización y dependencia de las plataformas y las estructuras comerciales extranjeras se estima que

pues toda la producción cultural se ha visto enfocada en esta dirección esta situación plantea nuevos interrogantes los derechos de autor condiciones de trabajo o la viabilidad económica

hay iluminadores técnicos de sonido maquilladores escenógrafos peluqueras

de múltiples disciplinas y especialidades con mucho conocimiento y años de experiencia participan junto con el creador

este grupo enorme de personas son los que ayudan y consiguen plasmar y dar esa solución

los oficios conexos a las labores de los creadores son una condición de posibilidad para la mayoría de las creaciones

cuando hablamos de las industrias culturales y recreativas no estamos hablando

en creación de empleo y proyección internacional este conjunto de industrias creativas y culturales

y setecientos sesenta millónes de ingresos cifras nada desdeñables que representan entre un tres y un cinco por ciento del pib pero

la mayoría de los artistas son trabajadores autónomos con un estatuto legal precario que carecen de ingresos regulares y no perciben remuneración alguna durante períodos prolongados

la situación hace que el monto de sus cotizaciones sociales no alcance un nivel suficiente para permitir

así como otro a tipo de prestaciones sociales esta precariedad laboral cuando hablamos de euskadi desafortunadamente esta es una situación y una norma general en el mundo si bien es cierto que las soluciones

en el resto de trabajos y es lo que se fomenta desde el estatuto de los trabajadores

y es su alta tasa de temporalidad la llamada intermitencia esta intermitencia es una peculiaridad laboral muy presente en el sector cultural y como tal viene recogida en la legislación

admite la contratación temporal como preferente en los trabajos artísticos

no garantiza el principio de estabilidad laboral como sí lo hace el estatuto de los trabajadores y por eso no es raro que un artista

una de las consecuencias sociales más dramáticas de los efectos de la pandemia ha sido la toma de conciencia de la fragilidad del sector cultural pese a las múltiples medidas adoptadas para su protección

ha quedado claro que hay un problema de base que impide que todas las personas que trabajan para el sector

y es que el principal problema con el que nos enfrentamos para que las ayudas puedan llegar a todas las personas ha sido que muchas trabajadoras del mismo no han sido consideradas como tales trabajadoras del sector cultural

o por no estar trabajando en el momento en que llegó la pandemia por eso desde elkarrekin podemos izquierda unida

de un registro tanto de artistas como del conjunto de trabajadores y trabajadoras que de una o de otra manera estén vinculadas al sector cultural

un registro vasco de artistas y oficios conexos de

la base de datos que proponíamos tiene una triple finalidad en primer lugar para quienes trabajan en la cultura les supondrá un lugar donde plasmar su vida laboral y contar con un respaldo administrativo

después de haber cumplido una serie de requisitos su inscripción en este registro podrá facilitar el acceso

por desempleo las bajas de maternidad o cualquier otra situación que se les dé

propia que tienen desde la institución debemos ofrecer seguridad y protección social en segundo lugar

y con ello será mucho más fácil determinar las necesidades elaborar encuestas o planear líneas de actuación y por último lugar el propio sector cultural también le servirá como una base de datos en la cual pondrá en relación artistas técnicos programadores

les ayudará a crear sinergias y como fuente de información para su trabajo

se hace imprescindible contar con los colaboradores adecuados tampoco hemos de olvidar que esta herramienta es una de las principales reclamaciones que se dieron en el estatuto del artista

para la seguridad laboral de los trabajadores intermitentes y para acreditar derechos sociales además se trata de un instrumento con el que ya cuentan otros países

el mundo artístico y cultural es un ecosistema social frágil que está en permanente construcción ahora es el momento de reforzar el sector de poner los medios para que el trabajo de décadas no se vea interrumpido

y este es el modo de defender los derechos universales y de participación

en este tiempo de absoluta incertidumbre es imprescindible la solidaridad con los

y si de verdad se desea transformar y fortalecer el ecosistema cultural el derecho a la cultura debe defenderse y visibilizarse más

y no solo con buenas intenciones eskerrik asko

no en vano la organización de las naciones unidas llama patrimonio inmaterial de la humanidad a aquellos hitos culturales que son

hablar de cultura es cómodo algunos le dan una importancia notable a la idea y se dedican a aumentar las partidas destinadas al departamento de cultura

la pregunta es qué es la cultura desde luego no hay una definición unívoca del término pero dado el lugar en que nos encontramos

que se ajustaría perfectamente al caso la cultura circunscrita y que definía del siguiente modo conjunto de aquellos contenidos culturales teatro música

cine folklore que pueden considerarse como circunscritos a efectos de tutela y promoción por instituciones tales como ministerio o consejerías de cultura

una idea donde el creador ha de adecuarse a los requisitos de la administración una administración cuyos líderes políticos parten de unos intereses e ideas concretas que mediante el mencionado departamento de cultura tratan de imponer a la sociedad qué proponemos desde vox dada la realidad del covid diecinueve creemos conveniente acometer una profunda reforma de la ley de mecenazgo una ley que abre el marco

por supuesto también compartimos la necesidad de dotar de ayudas extraordinarias al sector sector que ha visto interrumpida su actividad al igual que a tantos otros les ha ocurrido

civil mediante una ley de mecenazgo ambiciosa a su vez

los contenidos deben ser dirigidos a fomentar nuestra historia común a unir puentes entre la sociedad no podemos seguir por el camino de la crispación y la división
pues la historia nos ha enseñado en múltiples ocasiones que la unión hace la fuerza muchas gracias eskerrik asko martínez andrea

es el reconocimiento a todos los agentes concernidos en la esfera del ecosistema cultural

al menos para mi grupo para los socialistas la cultura y su entorno son un elemento clave en la configuración y en la cohesión social de una comunidad la cultura es una cuestión clave que atañe

una actividad que de una manera o de otra incide en la vida de todas las personas

desde donde debemos establecer el debate sobre las políticas culturales tanto estructurales como coyunturales que el sector necesita y nos reclama

el gobierno vasco al igual que el resto de instituciones comenzó a trabajar en todas aquellas medidas necesarias para paliar el impacto de la crisis económica que comenzaba a vislumbrarse

comencemos por hablar de las medidas coyunturales que se han venido implementando y sobre las que sin lugar a dudas

y sobre las que deberemos de seguir hablando en esta cámara son numerosas las ocasiones en las que ha quedado en evidencia el consenso mayoritario de este parlamento sobre las necesidades

que permitan paliar el impacto de esta dura crisis esta también ha sido y es preocupación en repetidas ocasiones manifestada por el consejero

en respuesta a varias preguntas se nos ha informado de la relación continua mantenida con los representantes del sector del servicio de asesoramiento al que posteriormente me gustaría

de la evaluación realizada por el observatorio vasco de la cultura para dimensionar el impacto de esta crisis de las medidas específicas para la ayuda económica a los profesionales del sector no quiero entrar aquí a repetir lo ya dicho en esta sede por el consejero los datos están recogidos en el diario de sesiones

espainiako gobernua ere lehenengoan du bertan egon da el sector no ha estado solo

con una programación intensa que ha permitido mantener viva la cultura en ese territorio histórico o la de gipuzkoa

también ha estado ahí la batería de ayudas del gobierno de españa a este respecto

y las ayudas para la acción y promoción cultural ambas promovidas por el ministerio de cultura y deporte

pero es que ayer mismo conocíamos que el instituto nacional de las artes escénicas y de la música que también es un organismo dependiente de este mismo ministerio de cultura y deporte ha concedido más de dos millónes de euros en ayudas extraordinarias a diferentes compañías de teatro

esta pandemia las diferentes compañías vascas dedicadas a estas disciplinas han logrado atraer un millón de euros en bizkaia novecientos mil euros en gipuzkoa

ikasi beharko dugu nadie se puede quedar atrás tenemos que estar continuamente vigilantes aprendiendo con rapidez de todas las incidencias que vayan surgiendo en el camino y así se lo pedimos al gobierno y a las demás instituciones los grupos que hemos firmado esta transaccional que adecúe periódicamente los criterios condiciones y obligaciones de las ayudas a la evolución y duración de la pandemia seamos activos pero también reactivos pero creo que este debate quedaría pobre si no adelantamos en él las más necesarias medidas estructurales que han quedado en evidencia tras esta crisis

es importante que también en ese caso en el caso de la cultura seamos capaces de buscar la oportunidad transformadora que se nos abre

es necesario reforzar el ecosistema cultural en aquellos puntos más débiles hace ya un año que el gobierno de españa comenzó los primeros pasos para la creación del estatuto del artista

y hagamos de euskadi un laboratorio pionero en esa materia el consejero de cultura

desde luego el compromiso de mi grupo es firme y trabajaremos para que de manera consensuada y acordada con el sector a la mayor brevedad posible

ezaugarrietako bat otra medida estructural

es la coordinación entre todas las instituciones competentes esto tampoco es nuevo y el gobierno es consciente de esa necesidad es preciso revitalizar el consejo vasco de la cultura definir de la forma más eficaz para generar las sinergias tan necesarias entre el gobierno

pero también con el gobierno de españa y la unión europea también estamos por ello en la transaccional al gobierno que en colaboración con las demás instituciones y con el sector

que revitalicen la actividad cultural pero no solo escuchar también formar acompañar y asesorar

pero el sector no puede verse solo es preciso que las instituciones lo acompañen lo asesoren el consejero nos habló de la experiencia de asesoramiento realizado por el gobierno vasco

ha sido bien recibida por el sector aprendamos también aquí de experiencias similares de acompañamiento y asesoramiento que también se vienen impulsando desde las diputaciones así por ejemplo es de reseñar el k bulegoa impulsado por la diputación de gipuzkoa un equipo que acompaña en los procesos de creación que facilita la información necesaria para la gestión

con el objetivo fundamental de favorecer la sostenibilidad de los mismos y la óptima profesionalización del sector kultura gure herriaren altxorrik preziatuena da

kulturaren esparruan lo que quieren los artistas es trabajar

de las declaraciones institucionales que no dan de comer y por eso la reacción inicial del gobierno fue la de hacer compatible esa economía

y salud en ese esquema un poco simplón no de salud dinero y amor son los tres pilares de la vida y lo que se trató de hacer desde un primer momento fue salir de esa tricotomía sin sentido que en este caso

estableció eh bildu de hacer apuestas excluyentes entre sí salud y economía se trató de aunar las tres facetas de la vida y creo

de las ayudas puntuales o coyunturales la apuesta que de verdad hay que poner en valor en el día de hoy ese fue uno de los principales errores políticos a nuestro juicio que se vivió durante la pandemia eta diru kontuekin bukatzeko europaren funtsak

en la primera comparecencia que tuvo lugar en esta misma cámara en la comisión de cultura

de coordinación sabe usted que la llave última de la fiscalidad la tienen las diputaciones que iba a emprender un trabajo de armonización de coordinación de reflexión junto con las diputaciones para hacer más atractivo